euro gutxiago egongo direla por lo tanto queremos saber si esos mil doscientos millónes de euros menos de los que dispondrá el gobierno vasco

o si tendrán consecuencias en las políticas de lucha contra la pobreza y la exclusión social en euskadi

más progresistas de nuestro alrededor leyes que han sido aprobadas con amplio consenso en este parlamento es necesario proteger a las personas más débiles

y para la inclusión social con amplio consenso parlamentario

tal y como explicamos en la comparecencia del seis de febrero ante la comisión correspondiente de esta cámara es lógico que el departamento de empleo y políticas sociales

para el presente ejercicio dicho esto y a falta de presentar el que será el proyecto definitivo de presupuestos sí nos gustaría aclarar que es el crédito destinado a este departamento y otra bien distinta las cantidades que van a ser destinadas a políticas sociales muy especialmente aquellas que se refieran a los servicios de carácter esencial tal y como ya hemos dicho públicamente nuestra intención es que el esfuerzo de contención se realice básicamente en el apartado de vivienda para seguir garantizando aquellas prestaciones

aquellas que se han demostrado cruciales en el sostenimiento de unas condiciones de vida y también para la cohesión social en euskadi me refiero naturalmente a la renta de garantía de ingresos a la prestación complementaria de vivienda y a las ayudas de emergencia social y no olviden que estamos hablando de unas prestaciones que tienen que ver con la dignidad de las personas

en unas condiciones básicas y es que además quisiera trasladarles que la encuesta de pobreza y desigualdades sociales recientemente realizada por el departamento

en el año dos mil doce con datos del dos mil doce el setenta y dos coma seis por ciento de las personas que se encuentran en riesgo de pobreza real están percibiendo la renta de garantía de ingresos un sesenta y seis por ciento más que las que percibían en el año dos mil ocho

se va a mantener la cobertura de estas prestaciones no tenemos prevista ninguna modificación reglamentaria o presupuestaria más que la adecuación de las ayudas de emergencia social

y a los decretos siguiendo especialmente en este caso las recomendaciones del ararteko nada más muchas gracias eskerrik asko aburto jauna

como son la renta de garantía de ingresos la pensión complementaria de vivienda y las ayudas de emergencia social que además como muy bien ha dicho usted resultan cruciales

de toda sociedad que quiera seguir avanzando beraz mila esker sailburu jauna berriz

quisiera trasladarles que en las prestaciones sociales básicas

lleguen a sus destinatarios es importante garantizar que lleguen en el tiempo en que se necesitan por eso les traslado un compromiso que asumí

en la que presentamos las líneas generales de nuestro departamento en este momento el cincuenta y cuatro por ciento de las prestaciones de renta de garantía de ingresos se resuelven

el resto fuera de plazo asumo el compromiso

el cien por ciento de las solicitudes se van a tramitar en el plazo establecido de dos meses

el sesenta y seis por ciento de estas solicitudes se resolverán en el plazo menor a un mes en estos momentos estamos resolviendo ya el ciento cincuenta por ciento de las solicitudes que están entrando nada más muchas gracias

no hay secretos en este primer encuentro le expuse los objetivos de país que presenté en esta cámara en mi discurso de legislatura el objetivo de adelantar la recuperación económica y la creación de empleo

el objetivo de avanzar en un nuevo estatus político para euskadi ni más ni menos

en esta cámara el día doce de diciembre y porque los he compartido también personalmente con usted eskerrik asko

betidanik hemen ez dago sekreturik respeto y siempre he respetado este parlamento al que he escuchado y escucharé y sé que soy el representante de todas las sensibilidades aquí representadas este parlamento en el que presentaremos nuestras propuestas

zurea da hitza bien gracias

lehendakari su partido en la oposición en la anterior legislatura hizo prácticamente imposible tramitar el proyecto de ley municipal de euskadi que el gobierno anterior remitió a este parlamento ahora y por desgracia desde el gobierno han vuelto a impedir que se pueda debatir como pretendíamos con la toma en consideración de una proposición de ley que mi grupo presentó en esta cámara al gobierno de su partido que es el de la emergencia nacional

según constatan los propios representantes de los ayuntamientos sean por cierto del color ideológico que sean estos

a lo que saliera de la reforma de la ley de bases de régimen local que prepara el gobierno de rajoy pese

a sus contenidos porque de acuerdo con lo que ya se va conociendo esa reforma atenta claramente contra la autonomía local devalúa la capacidad política de los ayuntamientos y cuestiona claramente las competencias de nuestro autogobierno no entendemos por eso señor lehendakari que su gobierno tan dado a pedir transferencias al gobierno central sea en esta ocasión tan timorato y tan sumiso al gobierno de rajoy a la hora de ejercer las competencias propias y por eso le preguntamos señor

de remitir a este parlamento el proyecto de ley municipal de euskadi o si quiere se lo preguntaré de otra manera sigue usted manteniendo señor urkullu que su gobierno tiene que esperar a lo que decida el gobierno de rajoy

como por cierto le han pedido reiteradamente los ayuntamientos vascos e incluso la propia presidenta de eudel porque señor urkullu a quién va hacer usted caso a los ayuntamientos vascos
o a mariano rajoy muchas gracias eskerrik asko pastor jauna jaurlaritzaren ordezkariak dauka hitza

legebiltzarburu andrea señor parlamentario yo creo que más que

impedimento por parte de la oposición para que se aprobara la ley municipal lo que

una incapacidad que se puso de manifiesto en esta cámara tanto por el retraso

total prácticamente de consensos imprescindibles por otra parte que se puso de manifiesto cuando se presentó la iniciativa usted nos pregunta

mire todo proyecto ley y de manera especial un proyecto ley que como este tiene por objeto o pretende regular una pieza

del entramado institucional vasco ha de tramitarse a través de un procedimiento que incluye necesariamente una serie de trámites pero tantos que no son arbitrarios no son caprichosos están previstos por el legislador para asegurar el acierto

además de redactar el articulado hay que someterlo a trámites de negociación consulta audiencia además de

todo esto usted lo sabe bien no se hace de la noche a la mañana todo esto requiere tiempo

porque algunos trámites tienen plazos y porque en otros casos conviene que los trámites

sin prisas sin precipitaciones y me pregunta cuánto tiempo significa eso mire

esta cámara aprobó por unanimidad que el gobierno había de remitir a la cámara un proyecto de ley

meses en la pasada legislatura el gobierno socialista empleó doce meses para

desde la recepción de las bases de eudel porque si tomamos como referencia la primera comparecencia a la consejera en la que prometió este proyecto ley no son

mi primera comparecencia tuvo lugar anteayer yo no voy a pedir veintisiete meses no tantos

que esta misma cámara consideró que es referencia razonable para presentar este proyecto durante las dos anteriores legislaturas entre doce y entre quince meses en ese marco me moveré y eso es lo que pido a la cámara

con lo que haga la ponencia que hemos constituido también o que se va a constituir para hablar del marco institucional algo tendrá que decir también en relación con el nivel institucional municipal el marco institucional y no sería bueno que chocaran aquí dos iniciativas en las que pueden producirse

necesario y conveniente acompasar la dinámica de ambas iniciativas

lamento que no me ha contestado el lehendakari pero en cualquier caso usted hace una especie de ejercicio de amnesia histórica porque se le olvida algo ustedes han estado más de treinta años gobernando este país fíjese usted si son años muchos más de veinte meses y de veintisiete

a esta cámara en multitud de ocasiones una ley municipal y no han querido hacerlo porque no había voluntad política por parte del partido nacionalista vasco de abrir un melón que a ustedes les suponía quiebra interna dentro del partido nacionalista vasco y no se puede venir a esta cámara hablando de los trámites de un proyecto porque usted sabe que tiene un proyecto de ley en el gobierno vasco

porque entre otros eudel pidió sucesivamente reuniones para poder acordar y plasmar compromisos de cara a la ley municipal compromisos por cierto que todos ellos están recogidos en el proyecto de ley municipal que el anterior gobierno remitió a esta cámara por lo tanto no parte usted de la nada no parte usted de cero parte de un problema

que ha cumplido todos los trámites legales y no me diga usted que su partido no entorpeció porque encabezado por el señor bilbao

presentaron recurso tras recurso a la comisión arbitral para impedir que la ley llegara a tiempo

fueron desestimados por la comisión arbitral que dio el visto bueno a la ley y lo que yo no entiendo después es determinadas contradicciones con las que ustedes afloran permanentemente ustedes en el escrito en el que se niegan a hacer criterio desfavorable a la ley nos hablan de que hay que esperar por prudencia a que se apruebe la modificación de la ley de bases de régimen local que estaba preparando el gobierno y sin embargo estoy leyendo de hace

que el grupo del pnv de las juntas generales de álava exige

por el señor de andrés que defienda las competencias de las instituciones vascas y alavesas ante la reforma de la administración local del gobierno central en lugar de plegarse a las instituciones de rajoy

porque en materia de régimen local existen en vigor muchísimas normas básicas dictadas por el estado todas en período socialista muchísimas lo que usted me quiere decir a lo mejor es que las normas básicas del estado en el ámbito del régimen local hay que respetarlas cuando están dictadas por el gobierno socialista en madrid

tan importante como el cuándo es el cómo se traen las iniciativas a esta cámara

para traer su iniciativa pero tan importante insisto como el cuándo es el cómo

no trajeron ni consensuadas institucionalmente ni tampoco políticamente

ni tan siquiera con el socio del gobierno principal el partido popular dejó claro aquí a través de su portavoz garrido

pero con las diputaciones con ninguna por eso plantearon el recurso ante la comisión arbitral por tanto eso es lo que hay que evitar traer aquí iniciativas

en materia de seguridad es que se marche la guardia civil y la policía nacional

a todas horas por eso le pregunto que por qué le preocupa tanto a su gobierno la presencia de la policía

señor basagoiti la prioridad del gobierno vasco en materia de seguridad la expuso ya en su comparecencia la consejera de seguridad señor basagoiti a mí lo que me preocupa realmente es cumplir el estatuto de gernika me preocupa

me preocupa garantizar la máxima eficacia en las políticas de seguridad en euskadi todo esto me preocupa

y me preocupa que a usted no le preocupe esto gernikako estatutuaren defendatzaile bezala

bete erraza da por qué le preocupa a usted tanto que la policía nacional y la guardia civil inicien el repliegue en euskadi hasta adecuarse en número de efectivos para lo que realmente tienen encomendada su función en virtud de la asunción de responsabilidades

por qué le preocupa a usted que la ertzaintza se consolide definitivamente como policía integral dónde está el problema en el estatuto de gernika por qué no se cumple el estatuto de gernika

no podemos actuar como si nada hubiera pasado o como si nada hubiera cambiado vivimos el tiempo que siempre hemos anhelado por el que siempre hemos trabajado

en su punto tres son meridianamente claros en materia de seguridad

y la guardia civil estos acuerdos los aprobamos cuando sufríamos el terrorismo y no se han cumplido cuando sufríamos el terrorismo y no se han cumplido ahora no entiendo por qué su partido realiza planteamientos que siguen eludiendo su compromiso

y participará en la junta de seguridad tratará muchos temas pero su preocupación es la misma garantizar la seguridad de las ciudadanas y de los ciudadanos

que ayude a que podamos alcanzar un acuerdo a que podamos cumplir lo acordado hace más de treinta años cumplir lo acordado hace más de treinta años en otras circunstancias además

gracias por ponerme a mí de le hendakari y interpelarme a mí en la pregunta que le interpelaba yo al lehendakari

es cierto que eta no mata es verdad que eta no asesina pero eta aún existe y si no pone bombas es en buena medida gracias a la labor de la guardia civil

como lehendakari les tendría que estar al menos agradecido públicamente no se equivoquen las armas que sobran en este momento no son las de la ley para hacer cumplir la ley las pistolas y las bombas

y no otras que nadie se equivoque tampoco es lógico señor lehendakari que cuando más falta hace esfuerzos por la seguridad

común en euskadi según todas las estadísticas usted esté empeñado en tener menos agentes de cualquier policía lo sensato sería

y otras labores compartidas según estatuto y leyes las puede hacer la policía y la guardia civil lo sensato es que haya más agentes

con esos argumentos puedo llegar a la conclusión de que la verdad de todo este repliegue que tanto reclaman no es de seguridad ni de lógica

es de obsesión nacionalista contra la guardia civil y contra la policía nacional de seguir la rueda de batasuna y eso es especialmente injusto y desaconsejable en este momento en el que eta quiere hacer creer la patraña de que unas fuerzas de seguridad impecablemente democráticas son culpables de lo que ha pasado aquí lo que hace falta señor lehendakari es

a la policía nacional a la guardia civil y a la ertzaintza por lo que han hecho por lo que van a hacer y por lo que siguen haciendo por la paz o libertad

es que las policías hagan su labor en euskadi con todos los efectivos posibles para única molestia de los delincuentes

sigue sin contestarme por qué esa obsesión permanente con que se vayan las fuerzas de seguridad del estado eskerrik asko

señor basagoiti no lo interpelo a usted en calidad de lehendakari evidentemente

como presidente del partido popular del país vasco y representante del partido popular en españa con responsabilidad en el gobierno de españa

con un tema tan sensible no voy a tratar de juzgar

ni en su enfoque que no es el mío desde luego no es el mío

de lo que es el repliegue del porqué del repliegue de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado de la policía nacional y de la guardia civil no se trata de eso se trata de cumplir la ley se trata de cumplir el estatuto de gernika

yo simplemente le animo a que se trata de contribuir
a ofrecer un mejor servicio de seguridad a los ciudadanos y ciudadanas cumpliendo la ley cumpliendo el estatuto de gernika eskerrik asko lehendakari jauna

señor lehendakari el día catorce de enero hace ni mes y medio en una entrevista

formaciones políticas y terminó afirmando que habrá que avanzar

en europa porque los vascos somos más que la comunidad autónoma vasca estas afirmaciones señor lehendakari en nuestra opinión cuestionan la legalidad vigente dan alas a los que defienden abiertamente la independencia y condicionan

el nuevo gobierno vasco estos objetivos y estas propuestas señor lehendakari deben ser aclarados en sede parlamentaria para que el conjunto de la sociedad vasca

a qué atenernos conozca realmente los planes de su gobierno el señor erkoreka hace unos pocos días decía que es un momento propicio para que el parlamento retome el debate sobre el autogobierno vasco estas cuestiones en definitiva señor lehendakari deben aclararse para que el conjunto de los parlamentarios sepamos a qué atenernos

conozca de primera mano cuáles son las intenciones de su gobierno en esta materia en definitiva yo le pregunto cuáles son sus proyectos respecto a un nuevo estatus de autogobierno
que lleve a la construcción de lo que usted llama una nación vasca en europa muchas gracias eskerrik asko maneiro jauna erantzuteko

señor maneiro conoce usted de primera mano el proyecto de este gobierno lo he expuesto con claridad y transparencia en esta misma cámara y lo que es más importante he comprometido avanzar en este proyecto de la mano de esta cámara

le voy a reiterar lo que pienso y lo que declaré aquí como compromiso de legislatura

de actualizar nuestro estatus de autogobierno sobre una base acordada y compartida por todas las sensibilidades políticas aquí representadas este es el compromiso de nuestro gobierno queremos que euskadi crezca como nación

lograr el reconocimiento de la nación vasca este es nuestro proyecto

pero que también representa al sentir mayoritario de la sociedad vasca y creo no equivocarme en este punto si le digo que este es el sentir mayoritario de la sociedad vasca según

tenemos una nueva oportunidad y la sociedad quiere que la aprovechemos y que lo hagamos juntos si es posible beraz maneiro jauna aukera berri baten

lehendakari me dice que conozco de primera mano cuáles son las intenciones de este gobierno lo que pasa que yo le recuerdo lo que usted dijo en esa entrevista

hacia la construcción de una nación vasca en europa y por lo tanto nosotros queremos saber si efectivamente esto es así y cuándo van a comenzar a darse esos pasos porque nosotros pensamos desde luego que eso no es en absoluto una buena noticia sino todo lo contrario señor lehendakari euskadi ya está en europa

de construcción de una nación vasca en europa sume a euskadi en la incertidumbre yo le pido que se concentre y concentre a su gobierno en lo fundamental

a día de hoy euskadi empleo crisis económica paro desahucios estos son los problemas fundamentales a los que usted y su gobierno debe

abandonen definitivamente la senda del soberanismo yo le quiero decir que la independencia de euskadi nos llevaría al enfrentamiento nos sacaría de españa nos sacaría de europa nos llevaría a la ruina política a la ruina económica y a la ruina social nos dejaría fuera del euro creo que

a ninguna parte tiene usted que aclararse y decir con quién quiere caminar para sacar a euskadi de la crisis económica

yo le quiero decir que si ustedes optan por ese camino abrirá una brecha

si optan por ese camino romperá consensos romperá acuerdos impedirá acuerdos nuevos también en materia presupuestaria yo le quiero decir que si usted y su gobierno optan por ese camino de más soberanía

usted no podrá contar con upyd prácticamente para nada y eso

clarísimamente desde ya mismo muchas gracias eskerrik asko maneiro jauna

sabe usted cuáles son mis prioridades en cuanto al ámbito ideológico sabe usted también cuáles son mis prioridades y urgencias en cuanto a mi responsabilidad

y es que a más autogobierno a más bienestar a más bienestar más autogobierno más bienestar

propia realidad nacional es a lo que aspira la mayoría de la sociedad vasca dice usted que los objetivos y los proyectos deben ser aclarados en sede parlamentaria para que la sociedad vasca los conozca

deben ser decididos por nosotros y nosotras aquí en el parlamento vasco guri dagokigu hemen herriak eman digun ordezkaritza erabili

vivimos una nueva realidad en euskadi y también en europa podemos avanzar en autogobierno podemos avanzar en bienestar podemos avanzar sobre una base acordada

muy buenos días en primer lugar señor lehendakari antes de formular la interpelación quisiera agradecerle el hecho de que sea usted mismo el que

respuesta a la misma sé que podía haber delegado en uso de su derecho en cualquier

y le agradezco que un asunto de esta importancia como la que planteamos

de primera mano su posición como lehendakari el motivo que ha dado lugar al origen de esta interpelación es su decisión de crear

y convivencia que según explicó usted mismo pretende

ahora repartidos en distintos departamentos es decir según sus propias palabras para la simplificación de estructuras

en fin podíamos dar por buena esta explicación si no conociéramos no solo a las personas que formarán parte de esta secretaría sino lo que es verdaderamente más importante el objetivo para el que se crea según usted mismo ha expuesto para la revisión crítica del pasado

la convivencia si hoy contáramos con la presencia de un invitado a este pleno que no conociera absolutamente nada de la historia reciente de euskadi sin ninguna dificultad después de escuchar estos objetivos podía llegar a la conclusión de que hemos vivido un escenario de conflicto armado de bandos enfrentados que necesitan hacer una revisión crítica de sus actuaciones algo así como qué mal

no darse motivos para volver a matarse y fortalecer la convivencia porque esos dos supuestos bandos enfrentados se han hecho la vida imposible y no han querido convivir a usted le parece señor lehendakari que esto es

cincuenta años sabe que no que la realidad ha sido la existencia de una banda terrorista que durante cincuenta años ha matado ha secuestrado ha extorsionado y se ha ensañado socialmente contra aquellos que no compartían sus pretensiones políticas porque sí señor lehendakari han asesinado por motivos políticos por motivos ideológicos ese es el sello que dejaron en cada uno de sus asesinatos

sino que contaba con el aliento el apoyo la comprensión y la colaboración de personas que a veces

por ello entenderá que no podemos apoyar en estos términos y con estos objetivos la secretaría de gobierno que ha creado y quisiera en este momento referirme a las personas no es intención de mi grupo y mucho menos el estilo de esta parlamentaria

encaja como anillo al dedo con el objetivo que pretende su gobierno ya que es lo mismo que ha defendido hace años desde organizaciones que defendían el uso de la violencia con un protagonismo en el chantaje de lizaran del que creo que no se sienta muy orgulloso

yo no cuestiono la posición del ciudadano jonan fernández eso sí no la comparto pero la cosa cambia si sus posiciones son las que representan al gobierno vasco porque ahí no podemos aceptar que se dé por bueno

del que yo les hablaba mire señor lehendakari el desacuerdo del partido popular del país vasco con su decisión

en el cambio que estamos percibiendo en el partido nacionalista vasco con iniciativas que se han debatido en este parlamento

y que nos devuelven a periodos que pensábamos ya superados porque fíjese

de su gobierno y a ninguno de ellos le he oído decir ni una sola palabra en relación con algo que es fundamental y que debe ser liderado por cualquier gobierno democrático

su deslegitimación la deslegitimación del terrorismo deslegitimación en los términos recogidos en el artículo nueve de la ley de reconocimiento y reparación de las víctimas del terrorismo y permítanme señorías que en este momento

para reconocer a dos víctimas del terrorismo que hoy precisamente vamos a homenajear como son fernando buesa blanco y jorge díaz y

a un acto de la fundación fernando buesa que se titulaba qué significa deslegitimar el terrorismo y allí se decía que

porque aquí no hay una guerra y lo que tenemos que defender es la libertad atacada por el terrorismo y hablemos también

lo que es la principal violación de derechos humanos que se produce en el país vasco señor lehendakari vemos a este gobierno empeñado en trazar la pista de aterrizaje que eta viene reclamando desde hace tiempo

y para ello le bailan el agua a los verificadores y como también se les conoce enredadores invento también del mundo de eta para seguir en una estrategia de trasladar responsabilidades me da igual el nombre pista de aterrizaje

y no van a parar en ese empeño y están imponiendo sus condiciones

que solo reside en ellos al estado de derecho a la democracia y a los que hemos combatido a eta buscando que nosotros hagamos lo que ellos no quieren hacer la constitución de la ponencia en el parlamento es un claro ejemplo

y lo que en breves minutos se va a producir en este parlamento es otra

para que el mundo de eta no tenga que asumir su responsabilidad sino que seamos nosotros

para no tener que pasar por caja señor lehendakari le interpelamos para conocer

o por el contrario al servicio de la memoria verdad y justicia que merecen las víctimas

enzarzarme en una cuestión para la que no tengo ninguna intención y por lo tanto le voy a negar la mayor

y le invito a que honestamente analice las palabras del portavoz del gobierno vasco esta misma semana en rueda de prensa y le invito a que de manera honesta también reconozca la presencia del gobierno vasco de sus representantes

y no solamente de los consejeros o de consejeros del gobierno vasco sino de los miembros de la secretaría general de paz y convivencia a crear próximamente

señora quiroga insisto la paz y la convivencia la tenemos que tejer entre todas y entre todos

de alguno de los componentes de la secretaría general próxima de paz y convivencia y yo le digo que el perfil de los componentes en plural

a crear es el idóneo les conozco y reconozco su valía su honradez intelectual y su capacidad de trabajo conozco su trayectoria personal

que conforman la secretaría general de paz y convivencia en su estructura dirigente dependiente directamente del lehendakari tengo confianza en su capacidad de ser un equipo de trabajo competente y capaz de trabajar en equipo con un enfoque multidisciplinar un equipo que genere sintonía y que genere también y cree complicidades

soy muy consciente de ello el reto que afrontamos la oportunidad que tenemos nos necesita a todas y a todos señora quiroga me pregunta usted por los propósitos del gobierno en relación a la creación de la nueva secretaría de paz y convivencia mi primer propósito fundamental

compromiso total del gobierno y del lehendakari como lehendakari he querido asumir en primera persona la responsabilidad de la que será secretaría general de paz y convivencia

integrar todos los trabajos que en esta materia se han venido realizando con anterioridad lo dije en el debate de investidura también en esta cámara

me he referido en un sinfín de ocasiones a esta cuestión el trabajo con las víctimas también de los abusos policiales el trabajo con la extensión y la difusión de la cultura de la paz y de los derechos humanos el trabajo realizado

el trabajo para edificar el futuro instituto de la memoria sí señora quiroga también lo tengo muy presente y lo tengo muy presente en lo que tiene que ser el objetivo

se lo digo con claridad la vamos a aprovechar la tenemos que aprovechar es lo que nos corresponde sabiendo a quien corresponde y a quien compete la responsabilidad no solamente de ausencia de violencia

lo que tiene que ser un futuro de convivencia normalizada porque

y siento que este sentimiento es compartido implícitamente por cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país la sociedad vasca está casi en su totalidad comprometida con el rechazo a la violencia a la deslegitimación de la que usted menciona y de la que hemos hablado

desde el gobierno vasco presente quienes lo representamos en calidad anterior de responsables también del partido nacionalista vasco y de la defensa de los derechos humanos está comprometida la sociedad vasca con el reconocimiento de la dignidad humana un valor anterior o superior a cualquier idea o cualquier proyecto de carácter político la sociedad vasca está comprometida con los valores democráticos

y con la cultura de la convivencia y estos son los propósitos que animan al gobierno vasco que presido queremos dialogar queremos unir queremos acordar porque queremos aprovechar esta oportunidad y no vamos a dejar pasar esta oportunidad bakea eta elkarbizitza sustatzeko

gracias señora presidenta señor lehendakari las intenciones de un gobierno se miden por sus acciones y miren esta semana hemos asistido a declaraciones esperpénticas hemos asistido a las declaraciones de un miembro de eta distinguiendo entre víctimas usted qué cree

y que por eso hoy bildu va a estar presente en su homenaje y que el resto de las víctimas están matadas y bien matadas

o otras declaraciones de el dirigente zabaleta de bildu

a eta que entregue las armas pero que no se precipite es que esta es la realidad en la que estamos ahora es que lo que le estoy diciendo

es que eta no va a cejar en su obsesión en su objetivo de convertir su derrota en una victoria

es de la sociedad vasca es de todos aquellos que han dado la cara

unos más que otros pero esa es la realidad y no me tengo que ir muy lejos y puedo también mirar en las declaraciones de su propio gabinete

en este parlamento nos decía rápidamente y por una alusión de bildu que decía el representante de bildu algo así como que esto del traspaso de la competencia de prisiones como que se la traía al pairo que les daba exactamente igual lo que querían era

que se debía acabar con la dispersión pero a la vez a dos interpelaciones a dos preguntas de un parlamentario en esa misma comisión y qué iba a hacer el consejero de justicia para resolver los más de trescientos asesinatos no resueltos de eta

cuando hablamos de deslegitimación estamos hablando de estas cosas esto está claro

lo que le queremos plantear desde el partido popular es que estamos en un momento muy importante

señor lehendakari de que es una oportunidad pero tenemos que ver muy bien

y lo que no podemos tolerar es que el gobierno vasco entre en esa estrategia en la estrategia que también están planteando los verificadores no se puede hacer una exigencia al gobierno de españa y al gobierno de francia y a eta en pie de igualdad

y no se puede tratar a las víctimas del terrorismo y a los presos de eta en pie de igualdad y esto es lo que estamos denunciando le exigimos señor lehendakari que no contribuya a ese empeño de eta que no contribuya con su acción de gobierno a la preparación de esa pista

porque eta es lo que nos quiere decir que un momento

y es ahora cuando nosotros lleguemos cuando va a haber democracia de verdad eso es a lo que el partido popular no se va a prestar

que este gobierno tampoco se preste a eso tenemos que hablar de deslegitimación del terrorismo en los mismo términos en los que hemos hablado en los últimos años y ese es el cambio que estamos viendo en este gobierno y esto es lo que nos preocupa denunciamos y eso es lo que le exigimos mire nosotros por el contrario le pedimos que cumpla con la ley acordad en este parlamento la ley de reconocimiento a la víctimas y le exigimos señor lehendakari desde la legitimidad

como partido haber vivido lo que hemos vivido y haber sufrido lo que hemos sufrido no hemos llegado hasta aquí para ahora dar la razón a eta y que su derrota se convierta en una victoria muchas gracias

y me parece a mí que en mi primera intervención tampoco me ha escuchado o no me ha querido escuchar en relación a las declaraciones del portavoz del gobierno vasco en su

pasado en relación a las declaraciones a las que usted ha hecho mención del miembro de eta juzgado en paris

voy a insistir en decirle que la paz que no es solo ausencia de violencia

y que sabemos a quién corresponde esa responsabilidad y que seguiremos manteniendo la tensión en la exigencia de esa responsabilidad como también en otras exigencias la paz y la convivencia nos demanda a todas y todos sensibilidad

generosidad y nos demandan altura de miras y yo le reconozco como reconozco a otros grupos parlamentarios también el embate del terrorismo que han padecido como también

a que tal y como usted ha hecho referencia a todo lo que en este parlamento se ha hecho en relación a las víctimas del terrorismo sea honesta también con lo que ha sido el trabajo durante décadas en legislaturas sucesivas por parte de los representantes del partido nacionalista vasco del grupo parlamentario nacionalistas vascos en las ponencias de víctimas del terrorismo en la comisión de derechos humanos y también de cara a esa ley de víctimas del terrorismo

nos demandan generosidad nos demandan altura de miras y nos la demandan de forma colectiva pero también de forma personal a cada una de nosotras y de nosotros

y tiempo también nos demandan también acción y la paz necesita que demos pasos porque no podemos dejar de avanzar lo verdaderamente importante para mí es actuar

y para tejer también acuerdos de convivencia normalizada no vamos a cejar en nuestro empeño de exigir a eta

no vamos a cejar en ese empeño es una deuda que tiene eta pendiente con esta sociedad no vamos a dejar de trabajar en favor del reconocimiento a las víctimas

es una deuda que todos tenemos con quienes más han sufrido y padecido y con la misma convicción

necesita que sigamos dando pasos reitero necesita pasos

no estoy dispuesto insisto a dejar pasar la gran oportunidad soñada por la sociedad vasca esto es lo que he defendido y defiendo ante este parlamento esto es lo que he defendido y defiendo ante el gobierno español también y esto es lo que he defendido y defenderé también ante las instituciones europeas este es el propósito con el que nace

señora quiroga con un equipo que lleva una andadura de veintitrés días con un equipo que afronta la superación de una historia de décadas de terror de terror sí

una autentica prioridad social también como prioridad de la secretaría general de paz y convivencia y afronta la construcción de un nuevo tiempo de convivencia en paz para euskadi este es el sueño de nuestra generación

pido por lo tanto como lehendakari señora quiroga tiempo y pido confianza en las personas y en los equipos pido que concedamos la oportunidad

y en los valores que caracterizan a las personas que conforman el gobierno vasco en representación también del partido nacionalista vasco pido que concedamos la oportunidad al compromiso y al trabajo y pido que ayudemos entre todos a aprovechar esta oportunidad nuestro objetivo

integrar es recoger todo el trabajo realizado es dialogar para acordar egia esan quiroga andrea pertsonalki

efectivamente señor lehendakari le pregunto por las delegaciones del gobierno vasco

o embajaditas desconocemos a día de hoy aunque intuimos por donde pueden ir los tiros desconocemos

los delegados para las actuales embajadas son prácticamente los únicos nombramientos que no ha hecho si no me equivoco ha cesado a los anteriores pero no ha nombrado

de momento el gobierno vasco presidido

señor ibarretxe acabó su mandato con delegaciones de la comunidad autónoma abiertas en madrid bruselas chile méxico estados unidos

a cargo de los contribuyentes vascos era intención de ese gobierno en aquella época abrir nuevas embajadas en reino unido alemania francia y canadá para lo que en el presupuesto de dos mil nueve se reservaron

el gobierno anterior el gobierno socialista el gobierno del señor lópez

cambios unificó las embajadas de estados unidos y méxico añadiendo la competencia sobre canadá y mantuvo abiertas las de madrid bruselas

colombia a la que sumó venezuela y américa central y argentina con competencias sobre uruguay paraguay

desistió de abrir nuevas sedes las delegaciones supusieron un gasto superior a los dos millónes de euros en bi mila hamabigarrena además en la estructura de lehendakaritza se mantiene otra delegación

y una delegación en madrid que absorbe otro millón de euros el anterior ejecutivo se empeñó en vendernos la idea de que estas embajadas servían solo para facilitar la expansión la internacionalización y el asentamiento de nuestro

y de nuestros productos en países emergentes tal como él solía repetir a menudo en nuestra opinión eso no fue más que un lavado para

como ya dijimos reiteradamente en la anterior legislatura para ayudar acompañar

y su red de oficinas trece en los principales países del mundo y en las potencias emergentes y una red de consultores locales en otros cincuenta países que han venido realizando un gran trabajo

de estos temas la sociedad para la transformación competitiva cubre todo el mundo con sus delegados y consultores

asistidas el pasado año la spri apoyó y desarrolló más de quinientos proyectos de internacionalización de lo que no tenemos datos

las embajadas en este campo más bien intuimos que más bien hicieron poco o nada en este campo concreto vemos que el trabajo para la expansión internacionalización y asentamiento de las empresas vascas a lo largo y ancho de todo el mundo está perfectamente cubierto con las oficinas y consultores de la spri digo que son especialistas en estos temas mucho más que los delegados políticos que se nombran para las delegaciones por otro lado en los últimos tiempos

ha venido ofreciendo reiteradamente a las comunidades autónomas las instalaciones de las sedes diplomáticas del estado para reducir

nos parece una excelente idea sin embargo las comunidades autónomas siguen diciendo que no a esta

español señor lehendakari nos parece un asunto importante y queremos que nos diga cuales son sus propósitos respecto al futuro

si van a seguir abiertas si se van a utilizar como elemento ideológico y de adoctrinamiento como se hizo en el pasado si hay previsión de abrir alguna nueva embajada y si es así

el futuro señor maneiro es un tópico decirlo así pero es cierto que es global y el futuro de euskadi por lo tanto es global esta afirmación no es mía

la puede usted escuchar en las empresas en las universidades en los centros tecnológicos o de investigación como usted en la propia intervención suya inicial creo que implícitamente ha reconocido y la puede escuchar también en este parlamento señor maniero el futuro de euskadi no el de sus empresas ni el de sus universidades solamente

este país lo sabe desde los años ochenta y desde los años noventa

la internacionalización fue un eje estratégico y este país acertó hoy el cuarenta por ciento de la producción vasca se exporta al mundo

gure presentzia zabaltzea eta indartzea señor maneiro yo estoy convencido de que euskadi quiere y necesita tener presencia en el mundo

sus profesionales sus alumnos y profesores sus investigadores

económico y competitividad he participado en el foro del emprendimiento organizado por la universidad tecnun en donostia y un joven empresario me presentó su proyecto de ola artificial

y sabe como lo saben la mayoría de profesionales que su futuro está en el exterior me contó cuál es la ciudad europea en la que más

y nosotros que estamos exportando lo que es desde

pues nos llama la atención yo no me lo podía creer cuál es a su juicio la ciudad europea en la que más surf se practica no en la ciudad sino más surfistas tiene parís me decía ahora

ofrecer su producto en parís en europa y en todo el mundo y como usted comprenderá el objetivo de este gobierno es ayudarle a ellos sí desde las

también desde lo que es la proyección de euskadi proyección de euskadi que no es solamente sus empresas sus universidades bigarren ardatza indar guztiak elkartzea da

guztion indarrak elkartu behar ditugu indartsuagoak izateko necesitamos la aportación de todos para reforzar la presencia de euskadi en el mundo

tiene que predicar con el ejemplo nuestra estrategia es señor maneiro le respondo agrupar en una misma estrategia la acción de las delegaciones

las relaciones institucionales son importantes las relaciones económicas son importantes y las culturales también las relaciones exteriores institucionales

deben ir de la mano para ser más efectivas en un mundo más abierto y más global el tercer objetivo es incrementar nuestra presencia

comenzando por europa en cuyo proyecto de unión participó el primer lehendakari del gobierno vasco el lehendakari agirre desde sus primeros pasos euskadi es una nación lo hemos dicho antes también de esta europa unida y el gobierno vasco

vamos a seguir apostando señor maneiro por la presencia de las delegaciones vascas en el exterior

con los pies en el suelo conocemos obviamente las dificultades presupuestarias y nos vamos a adaptar a ellas pero a su vez sabemos también insisto que la economía vasca pero también la cultura también la universidad también la investigación necesitan ganar presencia y peso en el mundo nos lo demandan

global de las delegaciones vascas en el exterior en esta estrategia

este año con un diseño de actuación que se acomode a las posibilidades y disponibilidades presupuestarias actuales el presupuesto con el que vamos a contar va a ser menor obviamente por eso vamos a tratar de crecer en esta primera fase a base de gestión de concentración de esfuerzos de sinergias de actuación es posible y así lo vamos a hacer este es un primer momento en el que

el cinturón lo hemos dicho unas cuantas veces y también en cuanto al mantenimiento de las delegaciones vascas en el exterior pero prevemos una segunda fase de crecimiento porque cada vez van a ser más las empresas vascas con presencia en el exterior cada vez van a ser más los proyectos los servicios y los productos vascos con presencia en el exterior

muy positivo va a ser señor maneiro un signo de recuperación económica y de crecimiento esto es lo que tenemos que ayudar pero no solamente desde las oficinas de las spri

mirando también a la conexión con las oficinas de la spri en el ámbito económico pero mirando también a lo que es nuestra identidad nuestra cultura desde nuestras universidades desde

con el instituto etxepare y no lo olvidemos este es el objetivo que queremos y este es el objetivo por el que vamos a trabajar

la estructura de presencia y proyección exterior de euskadi impulsada por este gobierno vasco eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna jarraian maneiro jaunak

gracias señor lehendakari observo que usted recupera las ideas ibarretxe ideas por otro lado nunca abandonadas por parte del gobierno socialista vuelve otra vez a defender estas embajadas las delegaciones vascas en el extranjero para hacer una labor que nosotros podríamos definir como identitarias a favor de

nacionalista o a vender eso que usted llama la identidad vasca nosotros no estamos en absoluto de acuerdo con este planteamiento ya le digo una cosa es ayudar a nuestras empresas en el extranjero y otra cosa es tratar de vender el proyecto nacionalista o una determinada identidad fuera

y en el resto del mundo tratando de trasladar la falsa idea de que euskadi es algo así como un estado independiente cuando no lo es señor lehendakari euskadi no es un estado independiente y por lo tanto euskadi no puede tener estructuras de estado

y lo es más a día de hoy que euskadi diga o diga el lehendakari que vaya a seguir manteniendo estas embajadas insisto

y otra cosa es tratar de vender la idea fuera de euskadi de que euskadi es un país independiente

para la expansión internacionalización y asentamiento de las empresas vascas a lo largo y ancho de todo el mundo ya está

un gran trabajo durante todos estos años para el euskera y la cultura vasca el instituto etxepare y lo que usted plantea es seguir utilizando estas embajadas para tratar de vender eso que usted habla y nombra como identidad vasca nosotros

porque la representación política exterior del país vasco ya está cubierta por las embajadas de españa y por las oficinas exteriores de la unión

en los tiempos que corren de estrecheces presupuestarias de crisis económica de falta de liquidez plantear que se va a seguir manteniendo este gasto a nosotros nos parece

nuevamente el cierre de estas embajadas es un disparate que se mantenga gasto innecesario mientras se impulsan

estas embajadas en concreto en nuestra opinión son perfectamente prescindibles no las necesitamos no son necesarias no están

la correspondiente moción en todo caso parece que usted no tiene claro de qué presupuesto estaríamos hablando

intervención nos plantee este dato desde luego para nosotros es importante que en los momentos de crisis en los que nos encontramos el dinero público el dinero de la gente se utilice para garantizar el estado del bienestar

para mejorar la educación para dar mejores servicios públicos y sociales al conjunto de los ciudadanos insistir en el mantenimiento

o embajaditas para vender la falsa idea de que somos un estado independiente nos parece una muy mala idea y nosotros vamos a seguir denunciándolo

lehendakariak dauka hitza ojalá señor maneiro que
las delegaciones vascas en el exterior pudieran ser consideradas como embajadas

interpretación que tiene usted con respecto a las delegaciones vascas en el exterior

hacer referencia a lo que ha sido la última parte de su intervención en relación a las políticas sociales y ya habrá ocasión de debatir sobre el proyecto de presupuestos que apruebe el gobierno vasco en sesión de consejo de gobierno beraz

vamos a saber ubicar nuestra presencia adaptándonos a los centros de interés de nuestro país vamos a gestionar las sinergias de la acción institucional económica y cultural y vamos a adecuarnos a la realidad económica y presupuestaria del momento pero de la misma manera que estamos conociendo un auge del turismo en euskadi auguramos también un

va a fomentar y a acompañar este crecimiento económico universitario tecnológico o cultural la realidad de nuestro país señor maneiro nos la va a demandar así

la pregunta por formulada gracias eskerrik asko maneiro jauna erantzuteko

izan dadin ha tenido usted la oportunidad de conocer el proyecto del nuevo gobierno en materia de paz y convivencia presentado en esta cámara en la sesión de investidura por mí en calidad de candidato a lehendakari hemos tenido la oportunidad señor maneiro de reunirnos y de compartir mis ideas

me ha escuchado usted y le he escuchado a usted hemos intercambiado ideas y opiniones hemos hablado del pasado y del futuro discrepamos en el enfoque

una cosa confianza la sociedad vasca insisto lleva mucho tiempo esperando este momento y creo que no podemos defraudar esta expectativa sé que no es fácil lograr un acuerdo entre todas y entre todos pero con todo el respeto señor maneiro me va a permitir usted

lehendakari si no me equivoco la pregunta concreta que yo le hacía

que usted ha designado si se ajusta al perfil necesario para liderar la derrota definitiva e incondicional del terrorismo para nosotros en absoluto para nosotros jonan fernández no tiene en absoluto el perfil que requiere un puesto de esas características

que no votan a upyd y a muchos ciudadanos vascos les parece absolutamente incomprensible que se elija para desempeñar esta labor para liderar la derrota definitiva de eta a de las características y no solo del pasado sino de las características actuales del señor jonan fernández por lo tanto en nuestra opinión

en absoluto cumple con el perfil que un puesto de estas características a día de hoy debería requerir en absoluto no solamente

todas las personas pueden evolucionar y pueden cambiar ya le digo no solamente por el pasado sino por lo que simboliza el señor

al nombrar a una persona de estas características sobre todo y especialmente por eso ya digo

fue concejal de herri batasuna responsable de la coordinadora lurraldea

fue concejal de herri batasuna desarrolló una labor específica el señor jonan fernández fue y es el gran defensor de la negociación política con eta eso es lo que simboliza jonan fernández

piensa en la autovía de leizarán y en su propuesta de que los representantes políticos teníamos que negociar con eta para corregir una determinada obra y esto

y es un disparate que este gobierno elija precisamente a esta persona para dirigir y liderar nada menos que la derrota incondicional de eta qué mensaje están lanzando ustedes no ya a las víctimas del terrorismo a las que no represento obviamente sino al conjunto de los ciudadanos

es decir justo lo que nunca se debió hacer y mucho menos debe hacerse ahora se le elige como el máximo representante para conseguir es lo que nosotros pensamos que debería hacer quien dirigiera ese organismo esa estructura nada menos que para conseguir la derrota definitiva de eta ya digo el señor jonan fernández tiene el pasado que tiene simboliza lo que simboliza simboliza la negociación política con eta y cada vez que interviene en los últimos tiempos

básicamente lo que hace es pedir el acercamiento de los presos de eta o un cambio en la política penitenciaria por lo tanto a nosotros nos parece

error y este nombramiento además de un gravísimo error nos parece algo absolutamente incomprensible y así se lo décimos hoy a usted

señor maneiro le pensaba a usted más actualizado en el conocimiento y en la interpretación del recorrido vital de las personas pero

el máximo representante el máximo responsable soy yo y he adquirido un compromiso personal en esta materia y lo hago desde la voluntad de alcanzar un gran acuerdo

y lo hago con el compromiso de aunar voluntades y de aunar compromisos diversos hemos podido mantener un primer encuentro usted y yo hoy y necesitaremos seguro por lo que veo muchos más

confiemos en el recorrido vital de las personas confiemos en la estructura con voluntad integradora en la actuación

para la próxima secretaría general de paz y convivencia confiemos en los equipos de trabajo confiemos en nosotras y en nosotros mismos señor maneiro porque aquí en este parlamento será aquí las decisiones que afecten al futuro de euskadi también en esta materia conversaremos discutiremos pero es aquí donde decidiremos señor maneiro juntos con plena responsabilidad y en plena representación de la sociedad vasca también

es que estoy observando que se están adelantando todas mis interpelaciones y preguntas y parece que va a ser un pleno de control protagonizado por un servidor y tampoco quiero eso

pero plantear que haga todas mis intervenciones seguidas me parece excesivo

le pregunto por otro asunto en concreto las aportaciones subordinadas emitidas por las cooperativas eroski y fagor y comercializadas por diferentes entidades financieras efectivamente han sido varias las entidades financieras que han comercializado estos productos no nombraré a ninguna en concreto me gustaría conocer

qué puede hacer el gobierno vasco para atender de la mejor manera posible a las víctimas

las personas que han sido víctimas de estos productos financieros si usted habla con ellas están ciertamente irritadas y se consideran víctimas

y por lo tanto piden una solución concreta que se les saque del lugar en el que se encuentran que se les dé una solución que se les ayude

tiene que estar atento a las reivindicaciones de los ciudadanos estamos hablando de unos cuantos miles de personas si no me equivoco estaríamos hablando

en general este parlamento cada uno de nosotros y desde luego el gobierno tiene que tener la capacidad

suficiente como para poner encima de la mesa las posibles soluciones no es un tema sencillo lo sabemos y lo reconocemos no es un tema

es un producto financiero legal eso es cierto pero el asunto es cómo se han comercializado estos productos y además habría que ver como se han comercializado estos productos

es decir cliente a cliente incluso desde luego nosotros nos hemos reunido con decenas de ciudadanos o con representantes de decenas de ciudadanos que se sienten engañados que se han sentido engañados por diferentes entidades financieras que se les dijo una cosa y era la contraria o que no recibieron

y esta gente desde luego merece una solución

en el próximo pleno tenemos ya una iniciativa planteada espero sinceramente que haya un acuerdo más o menos amplio entre los diferentes grupos para dar una solución

a estos ciudadanos que se sienten claramente perjudicados no voy a definir ni explicar qué son las aportaciones subordinadas

preferentes no voy a explicarlo lo sabe usted seguramente mejor que yo conocemos de qué estamos hablando

qué va ha hacer el gobierno vasco qué ha hecho o incluso si ya ha hablado con estas personas que han sido afectadas
por estos productos financieros muchas gracias eskerrik asko maneiro jauna

ante el conocimiento de las quejas y consultas que no reclamaciones que se estaban recibiendo en kontsumobide en las oficinas municipales de atención al consumidor

inicialmente la tarea de recabar toda la información necesaria para poder dar una respuesta a las personas afectadas tal como planteaba el señor maneiro tengo que decirle

estas reclamaciones solo habían sido publicadas en los medios de comunicación es decir no estaban registradas en los cauces oficiales nos propusimos como le he dicho recabar la información necesaria para saber si se estaban produciendo vulneraciones de los derechos de las personas consumidoras o incluso fraudes

es cierto y conviene dejarlo claro que efectivamente la emisión de las aportaciones financieras fueron realizadas por las cooperativas eroski

con la correspondiente verificación de la comisión nacional del mercado de valores y se comercializaron a través de entidades financieras mediante la figura

es importante reseñar que se esta utilizando de forma equivocada

porque la definición que da de ambas la comisión nacional del mercado de valores

poco tienen que ver con las llamadas preferentes salvo que ambas deban de ser verificadas en sus emisiones por la citada comisión dicho esto

se hicieron en los año dos mil dos dos mil cuatro y dos mil siete y en el caso de fagor dos mil tres dos mil cuatro

durante este proceso de recopilación de información que planteo estamos recavando por parte del gobierno usted señoría ha presentado a la cámara una batería de iniciativas una proposición no de ley en la que insta a kontsumobide y por tanto al gobierno vasco

en el conflicto entre caja laboral y los consumidores afectados ha planteado también

y de la asociación de usuarios de bancos y cajas y también ha pedido comparecer ante la citada comisión una persona particular en representación de la misma asociación de afectados estará de acuerdo conmigo señoría en que más que conveniente es necesario en este momento esperar a la recopilación total de la información

para conocer la postura de las asociaciones y sobre todo las de esta cámara

delimiten el cometido del mandato a este gobierno a la realización

en defensa y reparación de los derechos de las personas consumidoras que hayan podido ser vulneradas estamos convencidos de que no se puede exigir a eroski que devuelvan el nominal de lo invertido a los llamados ahorradores porque las condiciones de las emisiones fueron claras no vencían ni podía exigirse salvo voluntad de las emisoras

en el caso de los bancos y cajas comercializadoras será necesario como ha planteado estudiar caso por caso

no veraz o falta de información y en ello estamos en caso de ser así

sí gracias señor consejero básicamente para darle las gracias y

nosotros lo que sobre todo queremos es que entre todos podamos dar la mejor solución posible es decir sabemos que es un tema complicado no queremos hacer demagogia

pero sí que queremos señalar que ha habido casos que según estas personas se han producido engaños o no ha habido toda la información posible y lo que queremos es que entre todos y el gobierno también trate de buscar la mejor solución posible creo que

judicial en todo caso creo que sería bueno que este gobierno que incluso este parlamento pudiera instar al banco de españa y a las entidades financieras a buscar una solución en definitiva nosotros queremos una solución para las personas que han sido injustamente tratadas y esperamos que entre todos podamos alcanzar